kolektiboaren benetako integrazioa lortzea con objeto de contextualizar el tema nos gustaría hacer un par de reflexiones previas a la formulación de la pregunta concreta lehenik eta behin

el artículo veinticinco punto dos de la constitución española establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas

nuestro grupo euzko abertzaleak tiene claro que toda la política penitenciaria tiene que tener como objetivo fundamental el de hacer efectiva la resocialización la reinserción social tal y como ocurre en los países europeos más avanzados y en la línea normativa marcada

entendemos necesarias iniciativas encaminadas a hacer posible dicha resocialización

a itinerarios sociolaborales que les capaciten para reinsertarse en nuestra sociedad en definitiva para que puedan vivir de su trabajo en el futuro y que no se encuentren en la tesitura de pensar en poder delinquir tras cumplir sus penas y salir de la cárcel

gernikako estatutua behin eta berriro ez betetzea aipatuko dugu sabemos que el gobierno vasco ha solicitado reiteradamente al estado español el inicio de las negociaciones para llevar a cabo la transferencia a las competencias previstas en los artículos doce

así como la organización y gestión de los establecimientos penitenciarios pero a pesar de tener derecho a ello en esta como en otras materias hay que denunciar el incumplimiento de una ley como el estatuto de gernika por parte de los sucesivos gobiernos españoles unos los del partido popular tanto en madrid como aquí hay que reconocer que han sido coherentes durante todos estos años

han postulado y ejercitado la insumisión sí la insumisión al estatuto negándose expresamente a su cumplimiento en esta materia y otros el partido socialista

dada su promesa electoral de asumiremos de acuerdo con el estado las competencias en materia penitenciaria recogido en uno de sus denominados cien motivos para el cambio pero en la primera comparecencia en comisión de la señora consejera de administración pública y justicia al objeto de explicar las líneas generales de actuación de su departamento en la pasada legislatura ya se encargó

donde dije digo digo diego y que para los socialistas esta era y es una competencia que tiene que estar en manos de la administración estatal por lo tanto

por el contrario el partido nacionalista vasco en su programa electoral recoge el compromiso de exigir la transferencia de instituciones penitenciarias en cumplimiento de una ley del cumplimiento del estatuto de gernika

el gobierno vasco asumiendo el compromiso con las personas y a pesar de no tener

y consciente de que las personas reclusas en las cárceles de euskadi una vez que cumplan sus penas van a salir a la calle y hay que ofrecerles alternativas vitales llevan años trabajando para facilitarles su reinserción social gure galdera beraz

zuzentzen dioguna honako hau da qué actuaciones concretas ha llevado a cabo el gobierno vasco en esta materia

eskerrik asko legebiltzarburu anderea señor zorrilla efectivamente como bien ha hecho notar usted

atribuye a euskadi competencias para la gestión de los centros penitenciarios ubicados en su ámbito territorial sucesivos gobiernos que se han turnado en madrid durante los últimos treinta y cinco años se han opuesto sistemáticamente a la materialización de esta transferencia ante esta situación lo más fácil para todos hubiera sido

vinculados a su reinserción social sin embargo afortunadamente no ha sido así y desde el año dos mil el gobierno vasco viene impulsando programas

que tienen por objeto facilitar la reinserción social la inserción socio laboral de las personas privadas de libertad para el momento en el que

y se enfrenten al desafío de tener que vivir por sí mismos buscando empleo

constar también en su intervención de que quien abandona la prisión sin oficio ni beneficio con frecuencia está inexorablemente abocado a volver a la prisión de nuevo durante los últimos quince años el gobierno vasco ha invertido cinco coma seis millónes de euros para contribuir a la reinserción

en muchos casos que se ha conseguido efectivamente que hagan un reconocimiento del daño causado y reconduzcan su vida integrándose plenamente en la estructura social y laboral el año pasado el año dos mil catorce estos programas a los que me estoy refiriendo permitieron

acogerse a proyectos personales de reinserción y en este contexto de la mano de numerosas asociaciones y colectivos del sector

que participaron en cuarenta y tres proyectos impulsados por treinta y uno asociaciones todas ellas de la red vasca

por poner un ejemplo hubo ocho salidas programadas y campos de trabajo ocho programas de alojamiento temporal cuatro planes de deshabituación para drogodependientes

y doce centros de orientación y acompañamiento de empleo visto el éxito de las iniciativas insisto durante todos estos años durante quince largos años ya y en expresión una vez más del compromiso que tiene el gobierno vasco con propiciar la reinserción social de las personas privadas de libertad que es el objetivo fundamental que deben perseguir

este programa lo mantenemos también el año dos mil quince y ahora mismo acabamos de sacar la convocatoria pública anual que va a permitir a las asociaciones y colectivos del sector

de este tipo para contar con el apoyo del gobierno vasco todo en el marco de los objetivos de reinserción social que deben presidir las políticas

debe ser el de procurar su reeducación y la reinserción social de las

con transferencia o sin ella lo cual no quiere decir que vayamos a dejar de exigir la transferencia eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

al señor zorrilla por aclararle algunas menciones ya que hoy no tengo parte en este debate y usted

decirle dos cuestiones sí solicitamos la transferencia de prisiones en la primera reunión que yo tuve en instituciones penitenciarias en el ministerio del interior en madrid

dos convenios que nos llevan a euskadi como comunidad autónoma a gestionar todas las penas alternativa a prisión todas las penas que se cumplen extramuros y todos los terceros grados y decirle también

la resocialización de los presos existe desde antes del gobierno lópez ha existido siempre en euskadi eskerrik asko gai zerrendako hirugarren puntua

y no a la oposición bien lehendakari la coherencia y la fiabilidad

y el asunto que origina esta pregunta creo que es solo un ejemplo el pasado trece de marzo

manifesté la preocupación de mi grupo por el retraso del gobierno vasco en la aprobación de los cursos de formación continua

que el patronato de la fundación había dejado preparados ya en el mes de diciembre y expresé también aquí la sospecha de que ustedes estaban dejando dormir intencionadamente este asunto

y así quedarse en la cartera con los millónes consignados le voy a recordar además lehendakari lo que me dijo el consejero de empleo el señor toña en primer lugar y contra toda evidencia aseguró que no había retraso alguno en la tramitación de unos planes que insisto

dejó listos ya en el mes de diciembre del pasado año a falta solo de su aprobación por el consejo de administración de lanbide y por el gobierno y anunció además que con seguridad serían aprobados en el consejo de gobierno del pasado martes día veinticuatro

que nada iba a condicionar la reforma de la formación que preparaba el gobierno del pp y que la convocatoria de los programas de este ejercicio no estaba afectada porque nosotros vamos a hacer

el gobierno de rajoy aprobó el viernes de la semana pasada el real decreto de ley que reforma el sistema de formación ocupacional y qué paso el martes en la reunión del consejo de su gobierno en el que debía darse vía libre a la convocatoria de los cursos pues que se quedaron sobre la mesa

erkoreka nos explicó en tono compungido eso sí que lo habían hecho por prudencia porque el real decreto de rajoy tiene carácter de normativa básica y puede afectar a los programas del gobierno vasco

y la pregunta lehendakari sigue siendo la misma es intención de este gobierno liquidar hobetuz como herramienta fundamental de la formación continua en euskadi

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi señor pastor la cuestión hobetuz ha estado muy presente en la agenda del gobierno vasco

y creo que usted tiene opción a saber que ha estado muy presente en la agenda del gobierno vasco y también mía particular porque hace ya bastantes meses que participé personalmente en una reunión de trabajo con hobetuz en la que ya se adelantó lo que podría estar sucediendo a hobetuz en el marco que estamos viendo en estos últimos días en ningún momento hemos tenido en el gobierno vasco en mente la palabra

desde el primer día hemos trabajado con hobetuz con todos los agentes que forman parte de su patronato y también con el gobierno español nuestro objetivo compartido ha sido preservar e impulsar la formación continua en euskadi hau da gure

este miércoles el gobierno vasco mantuvo un encuentro de trabajo específico con el gobierno español en relación a este tema trasladamos una propuesta y el encuentro fue fructífero

esta es la prueba de que nuestra intención no es liquidar nada sino arreglar y poder continuar ayer jueves y me refiero a lo que son los efectos de la sentencia no a lo que es el real decreto ley al que ha hecho usted mención ayer jueves se presentaron las conclusiones

y de forma consensuada hemos logrado reconducir una situación muy delicada y en relación a lo que es el real decreto ley usted mismo lo ha dicho sabe que tiene carácter retroactivo o efectos retroactivos no es intención del gobierno vasco

de hobetuz en relación a esa cantidad pendiente o no de devolución yo le he preguntado por los cursos de formación ocupacional y por su futuro yo hablé con el señor toña hace unos días

porque nos temíamos que el real decreto que no tiene efecto retroactivo lo que tiene es una disposición transitoria que faculta que se convoquen los cursos que ya están publicados cosa que no ha ocurrido

el tema de la convocatoria de ayudas y de momento señor toña siento decirle que le han hecho a usted hacer un papelón y el fiasco es tan morrocotudo que entiendo que no puede ser casual

en diciembre del año pasado estaba todo preparado para que el gobierno aprobase la convocatoria de cursos por qué no se ha hecho

impida que este año puedan salir los cursos porque el problema de fondo es a partir de ahora hay que adaptar la normativa para sacar los cursos y mi pregunta es

algún curso teniendo en cuenta los tres meses de retraso que llevamos y los otros tantos como mínimo

la normativa básica porque lo más probable es que este año dos mil quince sea un año perdido para la formación de personal estaría encantado de equivocarme señor toña usted me dice que no

pero hoy por hoy la sensación que tenemos es la otra la de un cierto postureo de este gobierno en la defensa del autogobierno muchas proclamas con el señor mas

autogobierno contra la recentralización del pp pero están ustedes encantados de que se aprueben medidas que recortan el gasto social e impiden

en los que se podría haber avanzado en el cumplimiento íntegro del estatuto de autonomía y el respeto al autogobierno de euskadi mire usted me ha preguntado

es por lo que usted me ha preguntado y es por lo que yo le he respondido en mi intervención haciendo referencia así al real decreto ley en mi última parte

como también a lo que es la sentencia que creo que es lo importante y nuclear también para lo que pueda ser la continuidad de hobetuz en todo caso le respondo cursos de formación sí este gobierno vasco va a convocar todos los cursos de formación que tiene previstos los va a convocar pero también le digo

que ponga en cuestión el cumplimiento por parte del gobierno vasco de lo que es una normativa básica del estado

en todo caso hobetuz es el foro en el que debemos analizar la situación

nos une a nosotros la voluntad de mantener y mejorar la apuesta vasca por la formación continua nos une también la voluntad de abordar una reflexión serena compartida

en euskadi y me refiero nuevamente a la sentencia porque esta sentencia es una nueva circunstancia que nos condiciona

contamos con la competencia de políticas activas de empleo lanbide es una realidad y además debemos analizar insisto los efectos del real decreto

y la pregunta insisto es intención del gobierno vasco liquidar hobetuz no la realidad es distinta en estos momentos

hay algo que no ha cambiado es la voluntad de invertir de forma concertada en la formación continua y en la intermediación laboral en euskadi eskerrik asko eskerrik asko

buenos días a todos buenos días lehendakari señora consejera usted ha señalado en numerosas ocasiones su malestar por que la junta de seguridad

y también es cierto que las funciones de la junta de seguridad órgano integrado por un número igual de representantes del estado y de la comunidad autónoma son muy importantes sus funciones

son la coordinación entre la ertzantza y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado si algo

es esa necesidad de coordinación entre policías para ganar en eficacia y es esa señora consejera es esa la finalidad que debe tener la junta de seguridad

la de mejorar la coordinación entre ambas administraciones y entre los distintos cuerpos policiales pero lo que no es de recibo señora consejera es lo que usted pretende querer convertir la junta de seguridad

su objetivo señora consejera porque usted antepone la política a la gestión por qué sino cuando tenía un ofrecimiento del ministro para poner fecha a esa junta de seguridad

fue poner de manifiesto la necesidad del repliegue de la policía nacional y la guardia civil eskerrik asko llanos andrea erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on no le voy a negar señora llanos su habilidad para gestionar la oportunidad temporal

será casualidad en cualquier caso usted me preguntaba si he solicitado la junta de seguridad mi solicitud de una nueva junta de seguridad está pendiente de respuesta desde el seis de marzo de dos mil trece fecha en la que tuve mi primera

no lo hace no lo convoca y hace bien porque sabe de qué debemos hablar y no quiere hablar de ello mire las comisiones de coordinación técnica

y las fuerzas de seguridad del estado llevan su propia dinámica no exentas de complejidad le confieso

acuerdan y resuelven pero la junta de seguridad no es solamente para eso la junta de seguridad es un órgano de impulso político para eso se creó y lo que yo solicito al

es precisamente que esa junta de seguridad nos sirva para definir el nuevo modelo de seguridad de euskadi eskerrik asko eskerrik asko

no sé si para que así pueda seguir diciendo que no se reúne o porque como le digo sus obsesiones son siempre políticas por encima de la eficacia en la gestión y eso ha sido su tónica desde el principio como lo es la tónica de su gobierno un gobierno más preocupado

y hoy aquí mismo hemos tenido prueba de ello y usted hace de esto gala especialmente señora consejera en su primera comparecencia en la que lo que nos debías explicar cuáles eran las líneas de actuación de su departamento

policía nacional y la guardia civil debía replegarse y realizó esta petición en un olvido intencionado

tienen cobertura legal para estar aquí y con una falta de sensibilidad absoluta

que ha dado la vida por los derechos y los vascos se ha dado la vida precisamente porque muchos se la han quitado para que se vayan y esas fueron sus primeras palabras señora consejera que se fueran que se fueran

desde luego no es una buena carta de presentación para crear un clima de colaboración y entendimiento pero a pesar de ello

hubo contactos entre su departamento y el ministerio para fijar asuntos que pudieran ser tratados en esa junta y asuntos sobre los que se podía avanzar a pesar de ello a pesar de esas primeras declaraciones

en un periódico ayer mismo este le ofreció el año pasado una reunión de la junta de seguridad

en los periódicos solamente quiere llevar sus reclamaciones políticas

que procurar la coordinación y la cooperación entre ertzaintza y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad de estado

su máxima prioridad que es garantizar la seguridad y la protección de los derechos y libertades pero no como le digo su prioridad la de su gobierno es la reclamación política por encima de la eficacia policial y empiezo a pensar que además es una forma de intentar poner un velo a la nefasta gestión de su departamento al fracaso

y además un reflejo de lo que usted entiende por negociación o se hace lo que yo digo o no me siento o no negocio nada más muchas gracias eskerrik asko

señora llanos sabe usted cuántas veces se ha reunido la junta de seguridad en estos últimos doce años tres veces

y la última de las reuniones tuvo lugar en junio del dos mil doce recordará el señor ares para hablar del dispositivo de seguridad de la vuelta ciclista a españa

cuando esté configurado el orden del día en el que está trabajando seriamente convocaremos esta junta de seguridad

y seguir avanzando la línea de alcanzar un acuerdo desde la lealtad institucional pactar y lealtad institucional parece que eso ya no es tan importante pero

para el grupo popular vasco sí le pregunto a usted sería importante la habilitación de la ertzaintza como policía integral en el espacio

y en acuerdos sobre formularios de adn y huellas digitales sería importante una mejor coordinación con las policías de otros países

sería importante también que definamos bien los espacios de actuación de la ertzaintza en materia

bilbao a juicio del grupo popular le pregunto sería importante

también para la sociedad vasca e incluso para las arcas públicas del estado una adecuación de las fuerzas de seguridad a la situación actual

para su desarrollo integral y para la normalización del espacio de seguridad de euskadi estos temas son importantes

porque yo ya he perdido la esperanza de que usted y él

lehendakari la justicia va a sentar en el banquillo de los acusados a veintiséis personas imputadas en el denominado caso de miguel veinte de ellas

delitos de prevaricación de omisión del deber de perseguir delitos cohecho tráfico de influencias blanqueo de capitales malversación de caudales públicos fraude a las administraciones públicas negociaciones y actividades prohibidas

falsedad en documento público contra la hacienda pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas los delitos por lo tanto son extraordinariamente graves

en dos mil diez en una entrevista radiofónica usted reivindicó

y dijo textualmente que cinco años han transcurrido para que lleguemos a la apertura de juicio oral en un tiempo curioso también se le olvidó decir que el juez instructor

por la falta de medios humanos ya que el departamento de interior y de seguridad no designaba los agentes necesarios para desarrollar correctamente las investigaciones yo le quiero preguntar si considera que el partido nacionalista vasco en todo este tiempo ha estado

en los últimos días yo le quiero preguntar si considera que usted y el gobierno han estado a la altura de las circunstancias y han respondido como debían y quiero también preguntarle a su gobierno la implicación del partido nacionalista vasco en el caso de miguel estamos hablando a fin y al cabo de una trama organizada de comisiones ilegales

relacionadas con el partido nacionalista vasco no podemos olvidar que el señor de miguel

en álava y que utilizó su correo electrónico de la diputación para reclamar una comisión

qué piensa usted en relación a esta cuestión han estado ustedes a la altura eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

a día de hoy no se produce ninguna afección en relación al gobierno

señor maneiro no habla de perjuicio patrimonial alguno para el gobierno vasco en cualquier caso le recuerdo que el gobierno vasco está personado en la causa

este personamiento como acusación particular garantiza nuestra defensa del interés público

que la actuación del diputado general de araba en el año dos mil diez y del partido nacionalista vasco cuando se conoció el auto del juez en el año dos mil diez fue diligente y ejemplar el diputado general de araba

y es además parlamentario electo en esta cámara su reacción fue inmediata y el mismo día en que tuvo conocimiento del tema actuó de forma contundente y clara y era en aquel momento no ahora cuando yo puedo hablar del partido nacionalista vasco que yo presidia el partido nacionalista vasco y deje claro desde el primer momento que los hechos

este fue el mensaje desde el primer momento y lo mantengo este no es un caso de financiación ilegal de un partido la reacción en dos mil diez fue

similar insisto en que no se produce ninguna afección en relación al gobierno y que estamos personados en la causa para defender el interés público

en primer lugar tengo que decir que ciertamente nos resulta muy difícil de pensar que el partido nacionalista vasco no tenía nada que ver en relación a esta cuestión estamos hablando de

en todo caso me quiero referir a algunas declaraciones que han realizado personas destacadas del partido nacionalista vasco y usted mismo en los últimos días el señor

ha dicho que la investigación podría tener un interesado impulso político ha dicho que estamos ante un maltrato al pnv

ha atacado al fiscal jefe de álava ha hablado de manipulación y ha dicho que hay un interés en tirar piedras contra el tejado del país como si el partido nacionalista vasco

quien está detrás suyo es decir el portavoz del partido nacionalista vasco en este parlamento ha dicho que hay una intencionalidad para que el caso aparezca en vísperas electorales y usted mismo ha denunciado la politización de la justicia y ha hablado también de impulso político por todo esto considero que ustedes no han estado a la altura en lugar de criticar al fiscal en lugar de criticar la justicia lo que tenían que hacer

inadmisibles eso es lo que tenía que usted haber dicho usted y el partido nacionalista vasco en lugar de tratar de criticar la justicia o condicionarla
criticar contundentemente a los corruptos cosa que ustedes no han hecho eso es lo que tendrían que haber hecho eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mire señor maneiro yo creo que me cuesta pensar que yo haya hecho mención a un interés en un impulso político usted se ha referido a mí y creo que yo no he hablado en esos términos

y al procedimiento judicial y quiero también invitarle a pensar si este gobierno el gobierno vasco por el que yo hablo ha sometido a una presión a lo que es el ámbito de la justicia mire no tengo mucho más que añadir a lo dicho primero voy a respetar y pido que se respete la presunción de inocencia de las personas usted ya las ha calificado segundo me he declarado contrario a la judicialización sistemática de la política y creo que es una obviedad y me declaro también contrario

de la misma yo no voy a participar en la dinámica que usted pretende porque no aporta nada en un caso que se está juzgando en este momento y que además ya fue objeto de una comisión de investigación específica en esta cámara y tercero

nosotras y nosotros vamos a respetar las decisiones de los tribunales en el momento en que se produzcan reitero que somos lo primeros interesados en la rápida clarificación de este caso por parte de la justicia los primeros interesados

en que la justicia se pronuncie y dicte sentencia y si el gobierno vasco en nombre del cual hablo

le garantizo que volveremos a actuar con la máxima rapidez contundencia y claridad eskerrik asko

consejeros y consejera buenos días a mí me gustaría que esta interpelación tuviera un espíritu constructivo

realiza el gobierno para ir neutralizando actitudes como las que se describen en el auto del juzgado de instrucción número cuatro de vitoria gasteiz en relación con lo que fue el conocido caso miñano caso kataia caso y otras muchas denominaciones el auto describe unas situaciones y comportamientos ligados a la comisión de determinados delitos ya se ha recordado prevaricación cohecho tráfico de influencias etcétera que tienen algunos de ellos

en actuaciones ilícitas en el marco de la actuación de personas

y de sus sociedades públicas formas de proceder que afectaban al dinero público y que se enmarcaban

públicos de los responsables políticos con empresas privadas con particulares fundamentalmente a veces con empresas y sociedades incluso sin trabajadores está claro que hoy estamos a la espera del definitivo juicio según ha decidido el juez que ha instruido la causa

también lo ha hecho para cómo se debe y se puede atajar desde los controles políticos y administrativos que esas circunstancias

o que sea mucho más difícil que se produzcan en la administración es cierto que hablamos de responsabilidades de personas pero no es menos cierto que pueden darse pasos y adoptarse medidas para que se puedan neutralizar esos comportamientos que ha descrito el auto y las actuaciones judiciales yo no voy a entrar en el terreno de los nombres o de los cargos sino en lo relativo a las actuaciones y a los esfuerzos de control posteriores no quiero

se ha tomado en serio las recomendaciones de esa comisión de investigación a la que usted ha aludido la comisión de investigación parlamentaria que desarrolló en dos mil once fundamentalmente y tuvo su informe final y su dictamen aprobado en sesión plenaria de esta cámara celebrada el diez de mayo de dos mil doce si eso

en la suya donde había que materializar desde luego esas recomendaciones no voy a recordar los trabajos

de investigación parlamentaria ahí esta el dictamen pero sí me quiero centrar en que ese dictamen además de conclusiones de análisis

y de responsabilidades realizaba una serie de recomendaciones al gobierno vasco recomendaciones que tienen que ver con transparencia que tiene que ver con mejorar procedimientos que ver con impulsar renovar mejorar controles en determinados aspectos relativos a muchas cuestiones ahí están contratos

fraccionamiento de contratos funcionamiento de la oficina de control económico motivación de las adjudicaciones de los contratos menores

análisis de las empresas invitadas y sus intereses concurrentes cuestión que es relevante en

se han analizado tanto en la comisión de investigación como en el propio auto judicial habilitación a la oficina de control para verificar la presentación de los

de referencia actuación de los parques tecnológicos y sociedades públicas como adjudicadores bien una serie de cuestiones que formaban parte junto con otro tipo de controles a los cargos públicos y políticos que forman parte desde luego

una labor importante de la investigación parlamentaria en aquel momento y del mandato que el parlamento hacía al gobierno para

análisis en esa transparencia desde luego al afectar la situación judicial

actuaciones llevadas a cabo en el seno de la propia administración vasca

y con el fin de conocer las medidas y propósitos del gobierno vasco para este tipo de actualizaciones que involucraban al gobierno en tramas dependientes de partidos o de ámbitos

interpelación en ese espíritu

en mociones y siempre será con el fin de recabar en este caso

por dónde se está avanzando para que esas cuestiones que hemos analizado en este parlamento y que está analizando ahora el juez no se puedan volver a producir por eso mismo le interpelamos en relación a qué medidas ha adoptado va a adoptar el gobierno vasco para seguir cumpliendo para cumplir las recomendaciones elaboradas

parlamentaria incluidas en el dictamen aprobado por el pleno de la cámara el diez de mayo del dos mil doce una vez que se valora también el auto

referido caso y qué propósitos tiene para adoptar decisiones conducentes a intensificar la transparencia y el control de las relaciones del gobierno con empresas y con particulares

qué propósitos tiene el gobierno para adoptar decisiones conducentes a intensificar la transparencia y el control en las relaciones del gobierno con empresas y particulares

profundizar en estas claves de las recomendaciones

las que afectan al gobierno y las que tienen que ver con los ámbitos donde la administración estaba involucrada en las materias objeto de análisis de esas investigaciones vuelvo a

es muy importante concretar es relevante y

el quebranto económico ahí está y el efecto negativo se produjo hay que recordar la recomendación una de aplicar de inmediato al objeto de mitigar el quebranto económico causado a las arcar públicas los procedimientos legales pertinentes para recuperar los fondos públicos abonados a las firmas kataia consulting errexal y ortzi muga

por parte de dichas empresas hubo contratos sin contraprestaciones se pagó dinero público y hay que saber

ese dinero que se pagó indebidamente son cuestiones que efectivamente forman parte de esas recomendaciones como algunas de las otras nosotros desde luego

en una moción consecuencia de interpelación vuelvo a decir en este mismo sentido constructivo

y dónde estábamos ahora en todas las cuestiones a las que yo me he referido antes

con los contratos del sector público contratos menores ese fraccionamiento yo creo la clave la publicidad la información el análisis de las empresas invitadas y sus intereses concurrentes hay cuestiones muy importantes que yo creo que el gobierno vasco trataremos de que

para ver las consecuencias de todas estas cuestiones que estamos hablando de la comisión de investigación y en definitiva de su materialización actual en el ámbito judicial en relación con estas cuestiones

yo he hecho un poco de menos al gobierno vasco en relación con este

referencias que se tiene que dar a la sociedad después de lo que ha sucedido con el auto nuestra obligación señor consejero y señor lehendakari que era

interpelación pero me parece bien que me la conteste el señor consejero es nuestra obligación como parlamento es velar

se cumplan las recomendaciones de este parlamento y porque los ciudadanos sepan que seguimos avanzando en la transparencia y en el control y algo muy grave ha pasado

y la sociedad quiere que se reaccione quiere que reaccionemos en el parlamento y quiere que el gobierno reaccione y de un impulso para que esas cuestiones

en recomendaciones que ya tiene este parlamento mejor yo creo que eso es lo que tenemos que avanzar este caso

fue un mazazo para muchos fue un mazazo para un partido

el gobierno fue un mazazo para la sociedad en relación con las claves en las que se movió y ha tenido muchas fases cuando se destapó en las fases

en la publicación del auto judicial y sigue teniendo repercusión por eso yo creo que a día de hoy es más importante que nunca es decir desde luego respetar la actuación de la justicia

llegará su momento pero nosotros tenemos que implicar al gobierno en un compromiso de regeneración y de transparencia en relación con cuestiones que

en este parlamento y lo haremos a través de esa moción queremos saber hasta qué punto se han cumplido

de esa comisión de investigación ha habido otras comisiones de investigación en este parlamento tengo que recordar la andadura de este parlamento comisiones de investigación algunas importantes también con importantes recomendaciones y sus referencias

las relacionadas con la irregularidades en el museo guggenheim balenciaga otras

las recomendaciones en las instancias al gobierno son casi tan importantes e incluso más importantes a la hora de neutralizar las actuaciones irregulares que otras cuestiones que

análisis parlamentarios y esas recomendaciones tienen que ser una hoja de ruta señor lehendakari señor consejero

presidenta señor lehendakari le pregunto por unos hechos que ocurrieron ya hace algunas semanas pero he querido mantener la pregunta porque

por la actuación tan lamentable que llevó a cabo creo que no puede dejar pasar esta oportunidad para reconocer los hechos ocurridos y reconocer que usted se equivocó

a los agentes que estaban protestando a las puertas del parlamento creo que usted no puede olvidar el cargo que ostenta el de lehendakari y creo que usted debe reconocer que actuaciones como las que llevó a cabo no se pueden volver a repetir

de cualquier político reconocer esto que se ha equivocado y que efectivamente tales hechos no pueden volver a ocurrir porque dan una imagen nefasta una imagen nefasta suya del cargo que ostenta del propio gobierno y no hace bien a nadie yo creo que usted ha tenido tiempo de pensar todas estas semanas

se equivocó todos nos equivocamos señor lehendakari yo el primero y no pasa nada por reconocerlo públicamente yo creo que su actuación de enfrentamiento

una serie de reivindicaciones que ellos consideran justas pues no beneficia a nadie no le beneficia a usted ni a su cargo ni al gobierno ni a la propia consejera presente lo cierto es que además intentó desprestigiar a los sindicatos al afirmar que gozan de un montón de liberados para pasar luego a calificar de guerra su estrategia sindical pasó luego al victimismo al considerar que sí le falta el respeto y finalmente anuncia

ante tanta falta de respeto institucional no es la primera vez que usted protagoniza hechos semejantes de verdad señor lehendakari reconozca que usted actuó mal pida perdón discúlpese y comprométase a no volver a repetir actuaciones tan lamentables por su propio bien

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro le aseguro que pienso y reflexiono mucho sobre todo lo que digo y sobre todo lo que hago

son una guerra contra el gobierno ha puesto usted en mi boca determinadas expresiones que yo quiero matizarle porque a nada que usted atendiera y no ya a lo que

representantes sindicales dicen en las redes sociales sino a nada que usted atendiera a la hemeroteca y a declaraciones públicas

le cito tres fechas treinta de enero catorce de febrero seis de marzo usted mismo habría comprobado y habría concluido que yo simplemente me he limitado a reproducir los términos de escrache o guerra

simplemente creo que la ciudadanía vasca no comprende que se remita a los medios una nota como la del treinta de enero esta

enviada a los medios de comunicación pero si es necesario también lo reproduciré leo solo parte de lo escrito

no son solo los delincuentes también lo son la consejera y su equipo os vamos a perseguir

y no dicho por mí si quieren guerra la tendrán términos utilizados previamente a haberlos reproducido yo

sinceramente creo que es una desproporción injustificable

todos los límites de respeto institucional y del compromiso debido con la ciudadanía por parte de personas que son agentes de seguridad y servidores públicos mire

contemplado en la ley de policía del país vasco y le invito a que lo lea porque ha servido para que yo pensara y reflexionara antes de que dijera y actuara en orden a lo que he hecho y habla de respeto actuar con integridad y dignidad preservar el prestigio de la institución trato correcto

o respeto a las autoridades creo sinceramente que es una desproporción que quienes deben velar por la seguridad pública alienten escraches o se expresen
en términos injuriosos hablen de guerra enemigos y persecución de ahí mi actuación eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

ya señor lehendakari pero su actuación me habla de la actuación de los agentes de la ertzaintza de los sindicatos las cosas que han dicho o que han hecho yo no hablo de eso yo evidentemente no justifico todo lo que han dicho ni todo lo que han hecho me remito a cómo ha respondido usted usted considera que ha respondido adecuadamente usted considera que un lehendakari puede perder los papeles usted considera que un lehendakari debe enfrentarse de esa forma públicamente a unos

sindicatos usted considera que hizo bien de verdad usted no considera

no va a pedir perdón yo creo que usted debería reconocer claramente que efectivamente se equivocó y no pasa nada por ello y desde luego también le pido que negocie

los problemas internos que existen en ese departamento ya le digo señor lehendakari yo no justifico todas las actuaciones de los agentes yo no quiero entrar en eso yo le analizo su comportamiento como lehendakari nuestro que es y creo que efectivamente perdió las formas perdió la calma a mí me da la sensación que usted es una persona muy tranquila en general en fin hay veces que usted pierde las formas porque ya ha ocurrido en varias ocasiones no le gusta que le critiquen y un lehendakari tiene que estar preparado para que le critiquen tanto los parlamentarios como sindicatos como

todos nosotros tenemos que estar preparados para las críticas pero usted también y debe reconocer que perdió los papeles creo que debe pedir perdón por la actuación
tan lamentable que se dio aquel último día seis de marzo solamente le pido eso eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

lo que pueda ser faltar al propio código deontológico de la ley de policía vasca con actuaciones como escraches persecuciones términos de guerra eso es crítica

y creo que lo he hecho guardando las formas y no faltando el respeto

de negociación no imposición no es cierta primero porque el gobierno mantiene abierta la puerta del diálogo estos quince meses hemos convocado dieciséis reuniones de negociación

segundo porque las condiciones laborales son estables cuentan con seguridad en el puesto tercero por el esfuerzo que está haciendo la sociedad vasca

de doscientos cincuenta y cuarto porque el gobierno ha respetado los acuerdos entre los sindicatos y el anterior ejecutivo así el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo

se está cumpliendo el acuerdo sobre el servicio activo modulado se están cumpliendo los acuerdos de esta legislatura para regular todos los permisos respeto

ha provocado importantes destrozos en el panorama socio laboral español

y se despoja a los trabajadores de la protección de la autoridad laboral una reforma

del paro y hoy la inmensa mayoría de los que consiguen empleo lo hacen en precario mientras la inmensa mayoría de los trabajadores ganan menos y ha aumentado el número de personas a las que ganar un sueldo no les resulta suficiente para una vida digna esta es la consecuencia

este parlamento la hemos rechazado de forma reiterada por eso en este parlamento hemos pedido que la administración vasca no sea cómplice de esa reforma que se aleje de los mínimos de esa ley y que en el ámbito de su competencia contribuya a que los efectos de esa reforma no se sientan en las actuaciones públicas por eso se hace pertinente

de una empresa pública vasca que se ha comunicado formalmente la semana pasada

se ciñe a las exigencias de la reforma que el propio gobierno

la legislación actual prescinde de la autoridad laboral y deja en manos del empresario establecer los criterios del despido colectivo pero dado que hablamos de una empresa del sector público vasco le preguntamos cuál es el criterio del departamento de empleo en su condición de autoridad laboral de euskadi en relación a la emisión de algún criterio de actuación

jauna la postura de este gobierno en relación con la reformo laboral ya es conocida no la voy a repetir

es decir que en esta materia y en nuestra condición de autoridad laboral haremos aquello que la normativa nos marca porque

de legalidad es algo que todos los demócratas compartimos necesariamente nos guste o no lo que tenemos que aplicar la situación actual es la siguiente como usted sabe el diecisiete de marzo se registró ante la autoridad laboral en la sede del gobierno vasco en vitoria gasteiz el expediente del despido colectivo

ese expediente está en fase de análisis de estudio y de la documentación aportada sin que todavía se haya procedido a dar comunicación a los

de la inspección de trabajo porque sabe usted que hay treinta días de consultas entre la representación de los trabajadores y la dirección de la empresa y nosotros de momento haremos lo que tengamos que hacer como autoridad laboral y esperamos a que la buena fe en las relaciones y

en las negociaciones consiga un acuerdo y en su caso

aplicando la legislación pero yo lo que le quería preguntar es un poco más allí

en su calidad de responsable de empleo del gobierno vasco en su calidad de responsable y la autoridad laboral en el país vasco

su postura cuál es su opinión al respecto por ejemplo de emitir

le quiero decir o sea otra pregunta que le quiero también comentar cree usted que realmente

como usted bien ha dicho no se hayan completado todavía las negociaciones no se haya acabado ese mes preceptivo que hay para acabarlas

buena fe en estas relaciones usted como yo sabemos que en el proceso después de iniciado este proceso

otras catorce personas que no estaban incluidas en este

y que se incluyen a partir de junio de dos mil catorce usted

de actuación de buena fe usted cree que esas catorce personas

han tenido las mismas consideraciones han tenido las mismas oportunidades que los que sí se vieron afectados y conocían su situación en abril

que actúe en su calidad de representante de la autoridad laboral que también la experiencia que usted tiene en cuanto a facilitar salidas usted sabe que este ere de eusko irratia ha generado un conflicto importante en una empresa pública vasca lo que le estoy diciendo no

un poco más allí que usted ejerza su capacidad negociadora que usted ejerza su capacidad facilitadora para que
esta situación para que este ere no acabe profundizando el eskerrik asko unzalu jauna toña jauna zurea da hitza

atendiendo al principio de legalidad no se trata de cual es la opinión del consejero de empleo y políticas sociales no se trata de eso se trata de cumplir con lo que nos dice el artículo cincuenta y uno del estatuto de los trabajadores el artículo cuarenta y siete y el real decreto ley

no puedo hacer otra cosa en estos momentos le puedo explicar cuáles son nuestras competencias y posibilidades al respeto que por otro lado usted ya las conoce

comunicación que fue acompañada con la documentación que ha de entregar la empresa a los representantes de los trabajadores

debe examinar la documentación presentada y si observa alguna carencia

no le vamos a dar un trato diferente nosotros porque nadie nos lo consentiría ni nosotros a nosotros mismos

o a otra empresa de este país no le vamos a dar ningún trato diferente porque no se lo tenemos que dar

la que en un momento determinado emita su informe y serán ellos con plena autonomía los que ellos a juicio de la documentación aportada emitan el informe correspondiente

la empresa aunque sea una empresa pública decidirá si mantiene el expediente y lo comunica a la autoridad laboral

y no le puedo decir otra cosa más no vamos a interferir ni posicionarnos en esta cuestión de manera diferente a lo que ya se hace en otros tantos expedientes faltaría más n neutralidad y propiciar la buen fe propiciar acuerdos si son posibles y el respeto exquisito a la legislación
nos guste o no eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa iñaki oyarzabal de miguel

oyarzabal jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señora consejera

irregularidades pagos indebidos en relación con las nominas de los trabajadores del departamento de educación a primeros de este año

pudimos conocer denuncias de los sindicatos de la enseñanza que incluso amenazaban con llevar a los tribunales al gobierno vasco por errores en el pago de las nominas en los trabajadores de la enseñanza pública los representantes

amenazaron con actuar judicialmente contra su departamento contra el gobierno vasco si no se daba

errores sistemáticos detectados en las nominas de los trabajadores de la red pública muchos de los cuales según el sindicato

según la central que calificaba estos hechos de enormemente graves y de numerosas irregularidades nosotros efectivamente al conocer esos datos presentamos una pregunta una serie de preguntas a su departamento para conocer con detalle de qué

al parecer el sistema informático del departamento de educación tiene lagunas o eso es lo que dicen

ha dado pie a múltiples errores que se han generalizado no reflejando por ejemplo

a un trabajador muchas de las irregularidades detectadas son muy antiguas y se remontan señora consejera a más de una década atrás

de las cantidades detraídas de las nominas por esta causa han podido ser recuperadas según los sindicatos en algunos casos hay trabajadores afectados con cantidades que superan los seis mil euros siete mil euros incluso dicen que hay casos que pueden

de perjuicio para el trabajador al parecer los trabajadores únicamente han podido reclamar los pagos indebidos hasta hace cuatro años o cuatro años atrás por lo que muchos afectados

perder sumas importantes de dinero por eso se lo preguntamos en su momento le hicimos una serie de preguntas queríamos saber exactamente cuándo se enteró su departamento de qué estábamos hablando quién alerta el problema cómo efectivamente

responde este tipo de irregularidades en el sistema informático cuál es la causa que los origina las medidas que ha tomado su departamento para subsanarlo en este tiempo desde el momento en el que se conoce qué cantidades se han calculado más allá de lo que puedan decir los sindicatos qué cantidades reales se han calculado que se han dejado de pagar

habían reintegrado ya y a quiénes y efectivamente nos interesaba conocer

la solución que en conjunto iba a aportar su departamento

a los trabajadores se va a poder responder solo de las cantidades retraídas en los últimos cuatro años se va a poner responder de todas las cantidades retraídas incluso en aquellos trabajadores en las que

durante los últimos diez años eso es lo que queríamos saber es verdad que conocimos ayer después de un mes y apurando el plazo conocimos una respuesta escueta

de su departamento firmada por usted en el que efectivamente nos daba cuenta de que lo conocieron en diciembre de que han tomado medidas para tratar de resolverlo a lo largo del mes nos dicen que a día de hoy todas las discrepancias

saben de qué se trata de qué cantidades estamos hablando y nos dice en respuesta parlamentaria que van a resolverlo

con las que ustedes determinan en trescientos quince personas afectadas de su departamento nosotros desde luego queremos conocer efectivamente

no solo que ustedes van a responder al problema que lo van a hacer durante el mes de abril pero queremos saber

interrogantes que afectan a los trabajadores en relación con sus derechos si efectivamente

cumplir con los pagos no realizados sino que efectivamente

a producir qué medidas en relación con los sistemas informáticos nos pueden garantizar que esto no vuelva

zuk idatziz egin zenidan galderari erantzuna eman nionean efectivamente tal y como le respondía

es cierto que se han detectado algunas discrepancias entre los datos de registro y las nóminas de personal dependiente del departamento de educación política lingüística y cultura del gobierno vasco estas discrepancias afectan tan solo al componente de antigüedad de algunas nóminas esto es lo que comúnmente conocemos como trienios y en su mayoría

nominak eizuren bidez ordaintzeko en realidad este gobierno lleva años trabajando en la unificación de los dos diferentes sistemas de personal y nómina

mediante un sistema único y uniforme que incluye las particularidades propias de gestión de cada colectivo administración general justicia seguridad y educación permite además trabajar con el sistema de dato único es decir

produciendo efectos inmediatos en todos los módulos que deben ser afectados beraz ezaugarri horrekin sistemak abantaila handiak dakartza batetik datu bat

nominalizatuta daude todas y cada una de las discrepancias detectadas entre el registro y la nómina están cuantificadas y normalizadas a día de hoy así el número total del personal funcionario de carrera laboral y fijo aceptado es de trescientos once personas no trescientos quince

y todos los errores detectados han sido subsanados en concreto

atendiendo a lo que usted nos contesta por escrito nos preocupa que efectivamente se nos diga que se va a dar cuenta de los atrasos a los trabajadores

la posibilidad de que haya trabajadores que se queden sin cobrar importantes sumas de dinero

establecido y queremos ampliar esa información muchas irregularidades como le decía

se remontan a más de una década una década atrás y en el caso

se puede reclamar los retrasos de los últimos cuatro años por eso

si se va a poder recuperar la totalidad de las cantidades detraídas sin límite temporal y eso es lo que nos gustaría que usted aclare hoy aquí podemos garantizar a los trabajadores que van a recuperar todas las cantidades detraídas sí

si tenemos garantizado que la modificación en el sistema informático garantiza que este tipo de errores no se van a volver a producir y si efectivamente

esto que ha ocurrido va a tener algún tipo de incidencia en las pensiones de los trescientos once trabajadores aludidos
información que nos daba hace un momento muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko

hala ere ulertuko duzuenez prozesu luze eta konplexu baten aurrean gaude se comenzó primero por el personal de administración general de justicia y de seguridad y se incorporó también al proceso el pago delegado de los centros concertados en la actualidad un total de veintidós mil empleados y empleadas de la administración reciben ya su nómina a través del sistema

si todo va según lo previsto la nómina de todos los funcionarios y del personal laboral adscrito al departamento de educación política lingüística y cultura

en consecuencia no volverán a suceder este tipo de errores en todo caso no podemos perder la perspectiva de la dimensión real de las discrepancias detectadas

se ha detectado un total de trescientos once casos de un colectivo total de dieciséis mil

en su mayoría se trata de la falta de registro de un único trienio insisto a día de hoy todos los errores detectados han sido corregidos en registro

conforme a lo legalmente establecido es decir con una retroactividad de cuatro años para el personal funcionario de carrera y de un año para el personal fijo amaitzeko azaldu nahi dut orain arte

duela auzia los casos que han salido

con motivo de la implantación de un sistema único de gestión de personal estamos trabajando para que el nuevo sistema esté en pleno funcionamiento en el caso de educación en el mes de mayo y este nuevo sistema
va a reportar una mejor gestión de personal así como un menor margen de error por lo tanto esperamos que no se vuelvan a reproducir este tipo de casos eskerrik asko

egun on guztioi consejera durante su comparecencia del mes pasado respecto a la renovación del acuerdo con la fundación

pudimos comprobar que es un acuerdo con pocos avances que ignora el arte y el sector artístico vasco es más caro además reconoció usted que no se habían tenido en cuenta todas las recomendaciones que el parlamento vasco había aprobado respecto a la renovación de dicho acuerdo

y cito textualmente que se referían las recomendaciones incumplidas a aspectos propios y de funcionamiento del museo que habrá que tratar internamente en los órganos de gestión del guggenheim bilbao decía usted

para cumplir con las resoluciones de la ponencia del parlamento vasco sobre la renegociación del acuerdo del museo guggenheim bilbao

porque si hubieran querido hacerlo las hubieran planteado en la negociación con la fundación solomon para la renovación del acuerdo pero no lo han hecho

da pena ver cómo una y otra vez las administraciones vascas abordan la relación con la fundación solomon desde una posición medrosa

cuando me respondió por escrito que las consideraciones y recomendaciones del dictamen de la ponencia parlamentaria

firmado en diciembre de dos mil catorce por escrito en una respuesta oficial y usted misma en la comparecencia veinte días después tuvo que reconocerme que muchas de ellas ni se han tocado en la negociación y son más de la mitad que hacemos entonces le preguntamos al lehendakari

porque eso es muy grave consejera en fin en cuanto a los incumplimientos concretos no han cumplido ustedes más de la mitad de las resoluciones

a los dos aspectos sustanciales a los que apuntan esas resoluciones uno

y el otro se refiere al papel de euskadi en esa relación que incluye la capacidad de decisión de los intereses vascos y también la participación del arte y del sector artístico vasco en el

decía que para empezar no se cumple la primera resolución que se refiere al proceso

el parlamento pide que se renegocie el acuerdo de servicios

incluyendo el anexo tres de declaración de programación artística a fin de lograr un contrato más equilibrado

vasca y la fundación solomon eso es fundamental porque

el acuerdo de gestión se hubiera negociado de acuerdo con las nuevas bases acordadas lo que daría una fuerza mayor a la posición de la parte vasca

el acuerdo de gestión dejando para otra ocasión el anexo tres

lo que pretendemos porque negociar un anexo una vez aprobado el acuerdo principal sin haber establecido ninguna condición previa es una posición muy débil para una negociación y fíjese si es importante ese anexo que no han querido negociar

que el contenido de la programación de las exposiciones y los procedimientos de adquisición

y además en sus quince páginas no se refiere ni una sola vez ese anexo ni una sola vez al arte vasco

pero no se refiere una sola vez al arte vasco ha perdido usted así la ocasión de incluir al arte vasco en las exposiciones va a intentar incluirlo en la futura negociación del anexo tres y cómo si ha quedado la parte vasca en situación de debilidad

se podrá resolver exclusivamente desde euskadi como usted ha dicho fíjese

que la programación artística y las compras se harán de acuerdo con los principios establecidos

que no han querido negociar en el que queda claro que ellos proponen y nosotros pagamos basta leerlo en fin consejera tampoco han cumplido que la

porque puede tener que atender a intereses contrapuestos al dirigir el guggenheim bilbao y a la vez ser el responsable de la estrategia global de la fundación solomon de nueva york cómo va a resolver ustedes estos

evitar esa actuación dual que perjudica al guggenheim bilbao

cómo va cumplir también la recomendación seis que recuerda la obligación de dotar

de una colección de arte vasco y español contemporáneo adquirida con fondos de la solomon también esto es cosa solo de la parte vasca

compre lo que apenas ha hecho hasta ahora tampoco se cumplen las recomendación trece que pide la creación dirección artística por concurso internacional de meritos como la que tienen todos los museos del mundo indispensable para tener una colección propia coherente y para hacer propuestas solidas y complementarias a la de la fundación solomon

sobre la programación de las adquisiciones y de las exposiciones para todo eso no basta un equipo curatorial es imprescindible

la ponencia del parlamento vasco y en cuanto a la participación especifica del arte vasco y sin ser exhaustivo le voy a citar solo dos incumplimientos uno

y de calidad recomendación nueve cómo lo van hacer y cuándo

cómo lograra usted que haya una exposición bianual vinculada con el país vasco bien de un artista o de tipo colectivo va a organizarlo el guggenheim bilbao sin contar con la solomon cuándo lo decidirán

en definitiva todo el carácter vasco del museo se remite a seleccionar cada año a dos artistas vascos emergentes para que conozcan

mediante doce actividades en cuatro semanas y ellos se pagarán el viaje el seguro médico el alojamiento etcétera

toda la participación del arte vasco como resultado de la renovación del acuerdo impresionante varias recomendaciones de una comisión parlamentaria respecto a introducir el arte vasco en el guggenheim y una negociación entre el gobierno vasco la diputación foral de bizkaia

también se ve clara es verdad cuatro estudiantes durante unos tres meses que también se pagarán el viaje el seguro médico el alojamiento

para terminar la parte vasca no ha logrado la fuerza prevista en las negociaciones hay recomendaciones que no pueden abordar

porque ustedes han negado de raíz que se negociará usted lo ha dicho en la comparecencia pasada no han querido negociar eso porque es cosa de bilbao está grabado no es cosa de bilbao pues esto todo ni es solo cosa de bilbao ni se resuelve solo con bilbao ni es lo que decía la ponencia

el acuerdo que han hecho así que qué van han hacer ustedes para cumplir las recomendaciones de este parlamento consejera

mahi buru andrea señor reyes insiste usted en preguntar acerca de algo sobre lo cual este gobierno

el pasado seis de febrero sin ir más lejos comparecía ante la comisión de cultura euskera juventud y deportes para explicar los términos en que se había renovado el acuerdo de gestión para el guggenheim bilbao y en aquella ocasión insistimos

en que no se debía confundir el alcance del acuerdo renovado sin embargo usted vuelve a insistir hoy en mezclar dicho acuerdo con aspectos propios del acuerdo de mil novecientos noventa y uno le recuerdo que este era un acuerdo de servicios de desarrollo y programación para el museo guggenheim de bilbao ya sé que usted tiene mucho interés en la renovación de algunos aspectos propios de dicho acuerdo

tiene su propio momento ritmo y lugar y no correspondía en ese momento no intente confundir

lo que quiere decir es que en el momento de la renovación del acuerdo de gestión con la fundación solomon guggenheim

como trataré de explicar a continuación y el resto de recomendaciones realizadas por la ponencia corresponden a aspectos que se deben analizar debatir y en su caso decidir las instituciones en el ámbito local y no en nueva york

cuando por otro lado se empeña a reclamar una mayor autonomía y un mayor liderazgo por parte del museo guggenheim bilbao en cualquier caso y dado que insiste en el no cumplimiento de las recomendaciones de la ponencia trataré a continuación de explicar en qué medidas se ha dado cumplimiento las mismas

de colaboración mutua y de la aportación del museo de bilbao a la imagen internacional de la red guggenheim creo que está claro que no somos solo unos clientes de la fundación solomon guggenheim sino colaboradores necesarios de la red guggenheim y que la propia fundación solomon guggenheim tiene interés en que bilbao siga siendo parte de la red

el punto siete se refiere a la rotación de las colecciones que componen los fondos de la solomon fundation

mediante la organización de una exposición con obras clave y representativas

fundation en los siglos veinte y veintiuno durante seis meses cada dos años en el museo guggenheim bilbao

los puntos ocho nueve y diez no guardan relación directa con este acuerdo y por tanto los abordaremos más tarde

creo sinceramente que ese compromiso existe guggenheim bilbao es muy importante para los artistas y las artistas vascas

efectivamente renovar el acuerdo con guggenheim significa renovar la apuesta por un arte vasco más y mejor vinculado a la escala internacional

sare horretarako kide aktiboa izatea suposatzen du con las recomendaciones trece catorce quince y dieciséis

explicado con anterioridad son cuestiones que nos atañen a nosotros y de las que nueva york o la red guggenheim no tienen decisión en cuanto al punto diecisiete quisiera subrayar que este es un acuerdo que hemos firmado como ustedes todos saben

las instituciones vascas sin que haya habido disparidad de criterios ni desunión entre las mismas por tanto no hay duda de que esta recomendación se ha cumplido absolutamente

estos son señor reyes los aspectos que se han recogido expresamente en el acuerdo de gestión y como he dicho con anterioridad el resto de las recomendaciones escapan del ámbito de dicho acuerdo y por tanto no han sido abordados en la negociación para la negociación del mismo

en que esto no quiere decir que dichas recomendaciones no se hayan tenido en cuenta lo que quiere decir es que estas corresponden única y exclusivamente a nuestro ámbito de decisión somos nosotras las instituciones vascas quienes debemos reflexionar

estamos ante una nueva estructura de la relación con una mayor autonomía

y a nosotros nos corresponde decidir las líneas estratégicas y las pautas de actuación de nuestro museo en este sentido considero que la evolución cultural que el museo está viviendo en los últimos años

no haya apreciado ningún avance desde el dictamen de la ponencia en junio del dos mil doce son muchos los pasos dados

y no me quiero extender pero sí quiero enumerar algunos que considero significativos

que usted ha citado en relación a prestar más atención a la experiencia de lo artístico y de los creadores en más de dieciséis años el museo ha presentado ciento treinta y uno muestras sesenta y dos de la colección permanente y sesenta y nueve temporales

se ha desarrollado una variada serie de programas educativas de gran actividad dirigidas a escolares docentes familias y colectivos desfavorecidos

uno de los ejes en torno a los que gira la colección propia del museo guggenheim bilbao

la construcción del museo guggenheim bilbao llevaba aparejada la creación de una colección propia y una identidad singular que complementara los fondos de las demás colecciones en este sentido el museo ha logrado un extraordinario conjunto de ciento veintiocho piezas y setenta y tres artistas

que puede considerarse autónoma y significativa y cuenta con identidad propia además una de las prioridades de la colección propia es reflejar la presencia del arte vasco contemporáneo así del total de las ciento veintiocho obras que la componen treinta y siete han sido realizadas por artistas vasco de modo que quedan bien representadas

con la presencia de artistas como jorge oteiza eduardo chillida cristina iglesias

en cuanto a la parte curatorial propia el museo ha trabajado en los últimos años un discurso que incide en la identidad propia de bilbao

y selecciones de la colección propia así mismo desde el pasado doce de febrero está disponible en la página web del guggenheim

en definitiva señor reyes considero que el museo guggenheim está realizando una gran labor para fortalecer su personalidad museística

dotar de mayor visibilidad a la colección propia y al arte vasco contribuir al conocimiento del arte y los valores que este representa

gracias presidenta mala costumbre esta de no responder a las preguntas no solo que miente por escrito sino que luego no responde a las preguntas yo le he hecho una pregunta muy concreta

cómo y cuándo las va a cumplir porque usted misma dijo en la comparecencia que era cuestión de la parte vasca era cuestión del museo guggenheim de bilbao y se pone a hablar

quiere contestarme por favor a la pregunta un respeto a este parlamento qué va a hacer

de la ponencia parlamentaria esa es una pregunta muy clara en fin ya está bien fíjese dice usted que es que no tocaba pues le voy a leer que se lo he citado antes pero se lo voy a leer

la primera y fundamental que arrastra a todas las demás dice

una renegociación del acuerdo de servicios de desarrollo y programación para el museo guggenheim bilbao firmado en el noventa y uno incluyendo

de programación artística que permita un contrato más equilibrado en la toma de decisiones y no en régimen de franquicia entre la administración vasca y la fundación la renovación del acuerdo de gestión se haría acorde a las nuevas bases negociadas

la primera recomendación es hacer algo que usted no ha querido hacer y puede decirme pues mire no lo hemos hecho por estas razones que perjudican o no

por escrito y por viva voz por lo menos tenga la seriedad de decir las resoluciones de las ponencias de este parlamento no las está cumpliendo dígalo explique por qué debatamos sobre ello pero no me venga con lo que ha hecho en el acuerdo renovado y no se envuelva en el guggenheim que es

al éxito de las instituciones el recurso de quien no tiene argumentos el guggenheim va bien todos estamos de acuerdo y todos estamos orgullosos de él

a este gobierno la capacidad de decisión de la parte vasca en la relación bilateral

y eso no es que lo hayan negociado mal es que no han querido negociarlo

y por lo menos reconozca aquí como reconoció en la comparecencia que más de la mitad de las resoluciones por ese motivo

no las han cumplido bien el director artístico es fundamental se habla y además es de sentido común en la ponencia del parlamento de construir

museístico del relato museístico una colección propia

unas compras que se hacen porque la solomon propone porque aparece algo que merece la pena o alguien del equipo curatorial se lo curre no que haya una cabeza con responsabilidad

que plantee la estrategia de compras para tener una colección coherente para el guggenheim

bilbao qué pasaría si por algún motivo se rompe la relación con el guggenheim bilbao y nos quedamos

con una colección que no tiene coherencia que es escasa que es de aquella manera y un cascaron maravilloso

en el sentido de evitarlas cosa que no están haciendo el anexo tres del acuerdo al que se refiere la primera resolución que le decía

que se refiere a las políticas de compra y de programación artística le repito y ahí queda claro que ellos proponen y nosotros pagamos

porque no tienen más remedio y van a tener que negociarlo y eso no era objeto de una negociación previa para atar todos los cabos en fin

a arreglar el desaguisado de las resoluciones no cumplidas y cómo lo van a hacer eskerrik asko reyes jauna

yo soy la que le pide a usted respeto porque me parece que no lo tiene ni a esta cámara ni a mi persona por supuesto nuevamente le digo las recomendaciones

hemos incumplido le vuelvo a decir que no eran objeto del acuerdo renovado por lo tanto no se han tratado en ese acuerdo ez duzu ulertu nahi

que el acuerdo prevé a lo largo del dos mil quince que se revise la declaración de programación artística

pero volviendo a las distintas recomendaciones de la ponencia que no han sido abordadas que no incumplidas sino no abordadas en la negociación para la renovación del acuerdo

la misión del museo hace especial hincapié en su finalidad de contribuir al conocimiento del arte y los valores que este representa en los dos últimos años el museo ha puesto en marcha sendas iniciativas

y exhibir sus obras específicamente en una de las salas del museo por otra parte la presencia del museo ha propiciado la actividad de nuevas iniciativas y centros dedicados a la creación contemporánea y en general a la exhibición artística como bilbao distrito de las artes lo que estoy diciendo con esto señor es que se van cumpliendo las recomendaciones no es que hay que cumplirlas a partir de un momento concreto o acordarlas en un papel sino que se van desarrollando a lo largo del tiempo

ha aconsejado que la mayor parte de las obras del arte vasco y español fueran compradas por la sociedad tenedora incorporándose a la colección de bilbao

y desde el año noventa y dos se han incorporado a su colección más de veinticinco obras de esta categoría

en estos años el museo ha organizado más de veinte muestras sobre la obra de artistas vascos algunas de ellas en exclusiva como por ejemplo cristina iglesias eduardo chillida oteiza lazkano

además de otras exposiciones que incluyan mayoritariamente obras de artistas vascos y proyectos dirigidos específicamente a jóvenes artistas y comisarios vascos

sino que lo ha hecho con una periodicidad más que anual y no solo potenciando la muestra de la creación vasca contemporánea sino que la ha integrado plenamente en su programación artística y su colección

área artística formada por diecisiete personas incluyendo una directora museística tres subdirectores

organización de contenidos artísticos y personal de distintos niveles y perfiles técnicos que componen la plantilla estructural

así como una selección basada en méritos profesionalidad experiencia y formación acordes a las necesidades de cada puesto

desde el pasado doce de febrero está disponible en la página web del guggenheim la convocatoria de una plaza de para el museo guggenheim bilbao en el punto dieciséis

el modelo de gestión del museo se caracteriza por tener objetivo prioritario el de maximizar los niveles de autofinanciación procedentes en gran medida del sector privado en coherencia con ello son los representantes de las empresas y entidades que colaboran con la financiación del museo quienes obtienen en contrapartida una presencia en el patronato de la fundación

nuevamente estamos ante una nueva estructura en la relación con una mayor autonomía y un mayor protagonismo y a nosotros nos corresponde decidir

nuevamente le reitero que el museo guggenheim está realizando una gran labor para fortalecer su personalidad museística y está avanzando y lo va haciendo día a día no en un momento dado y en un documento sino día a día

zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señora consejera hablar de liberados sindicales es
realmente un tema tabú es muy complicado conocer las cifras

que es importante que la sociedad conozca exactamente de qué términos estamos hablando cuando hablamos de liberados sindicales

asignación de horas para labores sindicales para la adjudicación de liberados

del empleado público y la ley orgánica de libertad sindical pero aquí en el año mil novecientos ochenta y ocho ya el gobierno vasco aprobó

con los sindicatos que en la práctica aquí esto se iba a superar que quedaban superadas las leyes mencionadas

en el país vasco posteriormente el departamento de educación en aquel momento dirigido por ea negoció un convenio con los sindicatos en el que se vuelve a aumentar todavía más el número de liberados sindicales en la red pública otros acuerdos como el del año dos mil diez gobierno de patxi lópez también eleva aún más la cifra

de liberados sindicales en el país vasco usted anunció

los ciento dieciséis liberados de la enseñanza pública que cuestan alrededor de seis millónes de euros a una cifra próxima a los noventa noventa y dos

qué ha sido de eso qué ha hecho usted qué medidas va a tomar exactamente para reducir el número

señor oyarzabal en relación a la interpelación planteada sobre la reducción de liberados sindicales en la enseñanza pública ya en enero pasado el señor

erkoreka remitió por escrito a esta cámara una respuesta detallada a la pregunta formulada por su grupo relativa al ajuste del reconocimiento de crédito horario

y ejercicio de la actividad sindical el departamento de educación política lingüística y cultura

con objeto de dar cumplimiento a la declaración del consejero de justicia y administración pública

esta labor se ha llevado a cabo tratando siempre de mantener el equilibrio entre la necesidad de regularizar una situación que se venía arrastrando desde hacía mucho tiempo y la petición de los propios sindicatos

oyarzabal jauna zurea da hitza pero señora consejera usted
no me ha contestado usted no me dice tiene la determinación de reducir los liberados sindicales sí o no oiga es que las cifras cantan nosotros hemos preguntado

había ciento veintiocho liberados sindicales en dos mil diez en el dos mil once ciento treinta y nueve

en el dos mil diez se pasa a cuatrocientos dieciocho en el dos mil once en etib de cuarenta y tres a cuarenta y nueve

es que aquí cada vez tenemos más liberados sindicales es que el gobierno vasco

cómo puede fastidiar a los funcionarios cómo puede

que cada vez necesitamos más liberados sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores qué está pasando el gobierno vasco es el enemigo de

defensores liberados porque es que oiga es que van aumentando en todos los casos

la administración vasca ha pasado de setecientos setenta y seis liberados en el dos mil diez

podemos añadir además los dieciocho liberados en la enseñanza concertada

en la educación treinta y seis liberados en la universidad se habla ya de más de cincuenta millónes de euros

esto ya supone una irregularidad esto es un cachondeo son decisiones arbitrarias cada vez que ustedes quieren acordar algo con los sindicatos lo que están pactando por debajo de la mesa es aumentar los liberados y eso tiene coste para esta sociedad tiene coste en las arcas públicas cada negociación se convierte en un zoco

regaladas a los sindicatos por diferentes intereses

para las arcas públicas nosotros queremos que salga usted aquí y que nos diga si usted tiene la determinación de reducir el número de liberados sindicales que nos diga qué va ha hacer cuantos

si efectivamente el gobierno vasco tiene un compromiso en relación con eso si este cachondeo de aumentar cada año el número de liberados sindicales va a seguir

simplemente de acuerdo con los intereses de las centrales y con superar los apuros del momento de cada

de seguir avanzando en este camino y como le he dicho previamente este departamento viene trabajando desde hace tiempo con el objeto de dar cumplimiento a la decisión adoptada y ajustar el reconocimiento de créditos horarios

lo que recibimos fueron sendos escritos de las centrales sindicales manifestando su desacuerdo y oposición a dicha medida convocamos entonces una nueva mesa sectorial que tuvo lugar el veintitrés de diciembre de dos mil catorce en dicha reunión se trató un único punto del orden del día

y unos días después el veintinueve de diciembre de dos mil catorce se remitió

la remisión de la relación de personal que seguiría como liberado sindical a partir del uno de enero de dos mil quince una vez realizado el ajuste correspondiente idazki horretan

buenos días señora consejera hace aproximadamente un año esta cámara a propuesta del grupo socialista adoptó un amplio acuerdo en relación con la licencia deportiva única en el que se instaba al gobierno de españa a respetar las competencias que desde la constitución se otorga a las comunidades autónomas en materia de deporte

licencia deportiva única el gobierno de españa sin embargo ha aprobado finalmente el texto legal definitivo de la ley

y otras medidas de reforma administrativa que recogerá la implantación de la licencia deportiva única por medio de la modificación del artículo treinta y dos punto cuatro de la ley esta modificación fija la necesidad de licencia para la participación en cualquier competición oficial también las autonómicas señalando que esa licencia deberá ser expedida con carácter único por las federaciones autonómicas que estén integradas en la correspondiente federación estatal

en la cuantía aprobada por la propia federación estatal en este mismo acuerdo

de la comunidad autónoma vasca a fin de preservar la capacidad de decisión que le corresponde en este ámbito y que pudiera impedir

se nos informa que el ejecutivo remitió en diciembre de dos mil trece su valoración y propuesta al consejo superior de deportes en relación con este tema

en competiciones deportivas de ámbito estatal aparte de que el gobierno vasco como declara en esa misma respuesta parlamentaria

lo que le queremos preguntar desde nuestro grupo es qué otros pasos piensa dar para defender sus competencias exclusivas en materias de deporte teniendo en cuenta que no han sido respetadas con esta licencia

no obstante el gobierno central ha aprobado el texto legal definitivo haciendo caso omiso a la voluntad del gobierno vasco y de la mayoría de las federaciones deportivas autonómicas

manifiesta invasión competencial que supone la implantación de la licencia deportiva única

continuaremos haciendo cuanto esté en nuestras manos para luchar a favor de nuestras competencias exclusivas eskerrik asko

señora consejera que el gobierno estaba en contra de la licencia única hasta ahí ya llegábamos pero qué van a hacer aparte del enfado el pataleo el decir estamos en contra qué van a hacer

es estar todo el día dando la matraca en la defensa de las competencias autonómicas en tema de deporte poniendo las elecciones vascas

y cuando llega realmente el problema de que el gobierno de españa intercede en las competencias autonómicas usted se limita a mandar un documento en el que dice por qué está en contra

decir estamos en contra para acabar aplicándolo lo mismo usted sabe que se pueden hacer cosas como por ejemplo

a crear grupos de estudios del tema para ver qué se puede hacer desde la comunidad autónoma

es limitarse a decir estamos en contra para acabar cumpliéndolo todo que es lo que hacen ustedes siempre

o quiero creérmelo porque es lo que usted ha dicho en todas las intervenciones de este grupo refiriéndonos al tema pero qué es lo que va a hacer

una proposición no de ley en la que instaba usted a actuar y un año después estamos igual que hace doce meses en que usted dice que está en contra

entonces lo que le pido en esta pregunta de control al gobierno es que por favor nos cuente qué es lo que va a hacer

ya sé que usted está en contra ya sé que ha mandado un documento y ya sé que usted dice haremos todo lo que esté en nuestras manos qué está en su mano qué es lo que pretenden hacer

en contra y efectivamente hacer algo efectivo para que las federaciones aquí afectadas sepan qué les da su gobierno o van a seguir con la bandera de la selección vasca de futbol para no hacer nada

señora rojo este gobierno no ha descartado ninguna opción y por tanto no descartamos la posibilidad de recurrir al tribunal constitucional pero como usted también sabe todo recurso tiene sus riesgos tiene sus lados positivos y sus aspectos negativos y hay que valorarlo todo muy bien estamos en plazo de pensar hasta junio

la ley o no hacerlo asimismo este gobierno tiene abierto en función de dicha decisión de recurrir un proceso de negociación bilateral con la administración del estado para poder alcanzar acuerdos sobre las perspectivas de la interpretación o la aplicabilidad de la ley

está asimismo en plazo de pesar que tipo de soluciones y alternativas se pueden articular para el interés de la ciudadanía vasca

tendremos que dar los pasos que sean necesarios para la aplicación de esta ley que sea lo más beneficiosa o lo menos perjudicial posible para nuestra ciudadanía y tal y como hemos tenido que hacer desgraciadamente

ataques que por cierto han sido propiciados en ocasiones por la opción política de la parlamentaria que ahora nos cuestiona eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

y por lo tanto los especialistas de ambas sedes comparten funciones en la asistencia sanitaria bueno estamos viendo a lo largo de todo este proceso que está viendo

en relación concretamente a la forma en que se está realizando esta integración

todo lo referente a los problemas en el servicio digestivo del hospital universitario de álava tenemos que decir que son problemas derivados claramente de una mala gestión

este servicio y hay que decir que esta mala gestión que está repercutiendo en la organización está disminuyendo la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos

para solucionar ya de una vez por todas los problemas en el servicio digestivo del hospital universitario de álava eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

garrido andrea he comparecido en la comisión de salud y consumo de este parlamento

siempre he manifestado que el objetivo del proceso es mejorar la coordinación de todos los servicios mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y dotar a los alaveses y alavesas del hospital terciario que necesitan ha salido usted aquí y me ha hablado de problemas me debería usted hablado de el problema porque siempre me habla del mismo

izan el objetivo no ha cambiado debemos ser conscientes

importante con culturas diferentes aunque es un proyecto necesario y de futuro es una tarea que siempre va a tener problemas en este sentido es cierto que existe una situación a mejorar en el servicio de digestivo del hua

fundamentalmente el clima de relaciones laborales entre algunos de los profesionales

incluidos los partidos políticos surgen problemas muchas veces sin que la misión y los objetivos esenciales de la organización en cuestión

con más de dos mil ochocientos trabajadores también sucede

al que la dirección del centro le debe prestar atención pero quiero despejar cualquier duda sobre la calidad y seguridad de la prestación del servicio de digestivo cuando quiera usted analizamos los reingresos

sí señor consejero la autocomplacencia suele ser generalmente la excusa que uno esgrime o se saca de la chistera para no afrontar los problemas y también tengo que decirle

usted reconocía que estaba habiendo problemas de integración y que efectivamente había habido

hablaba incluso de conflicto por lo tanto no estamos hablando de un problema menor hay problemas y problemas pero usted en la comparecencia del veinte de octubre ya hablaba de un conflicto y la voluntad de la dirección del hospital de arreglar el conflicto yo lamento que hoy aquí usted

preguntado que es realmente qué va a hacer para solucionar el problema el conflicto al que usted se refería en el servicio digestivo

en la comisión del veinte de octubre está claro que estamos ante un problema enquistado

y que es un problema derivado claramente de una mala gestión y una mala planificación de este servicio problemas

personas que han hecho sugerencias en este servicio que han sido relegadas por hacer sugerencias en un ámbito constructivo en relación a las contrataciones una reciente pregunta respuesta por escrito nos dice claramente que han finalizado dos contratos

tenían esas personas por qué no han sido renovados esos contratos es una cuestión muy importante y por qué gente que finaliza los contratos no se renueva y se está incorporando gente

en definitiva señor consejero no sabemos los criterios de los ceses de las prórrogas se ha cesado a personas con más antigüedad usted tendrá que explicar

servicio y apartadas personas que tienen mayor antigüedad por no hablar de las vacantes se habla de que hay vacantes sin titular en la categoría de facultativo de

pero no existe constancia de su amortización y de su conversión de estas plazas por lo tanto esto nos lleva a la conclusión de que las decisiones en materia de contratación se rigen por la arbitrariedad y la conclusión también más evidente

hay que hablar de los efectos le he hablado de las demoras los datos que usted nos ha dado no son reales no se corresponden

los datos de las cifras de las citaciones no tienen nada que ver nos hablan de tres meses

o en el tema de los reingresos no se dan los motivos de los reingresos no es lo mismo un reingreso de un paciente crónico que de un paciente agudo con un alta previa temprana en definitiva señor consejero

servicio se está agravando un problema y lo que queremos es ya de una vez por todas soluciones eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

garrido andrea yo creo que interpreta usted mal los datos

se miden habitualmente si son a siete días o si son a treinta días del reingreso en el servicio de digestivo como bien me preguntó usted por escrito no hay ninguna plaza vacante que no esté reservada

no se ha amortizado ninguna plaza simplemente había contratos temporales

pues no se renuevan como en cualquier otra organización en el servicio de digestivo no hay ningún problema en este momento a la calidad del mismo y usted lo sabe perfectamente la fusión de organizaciones complejas que previamente han estado en competencia compitiendo un servicio con otro

tuvimos la experiencia del hospital donostia y nos costó tiempo también fusionarlo

donde trabajan muchas personas donde previamente han tenido jefaturas distintas

para llevarse bien y usted lo sabe me está hablando

y me dice que hay tres o cuatro personas en un servicio que en este momento no están lo suficientemente contentas y que eso afecta al clima laboral evidentemente nos preocupa

y en eso estamos pero el problema es ese señora garrido es ese